que ya se está trabajando en el diseño de un plan de empleo reorganización

que puedan existir en un futuro y poder darles respuesta adecuadamente en ese sentido ya se ha constituido un grupo de trabajo

y en relación con la planificación de los recursos humanos y la posibilidad de aprobar planes para la ordenación de los mismos

bestela gaitik aldenduko gara como decía antes

pudimos conocer también que se están manteniendo reuniones con la administración general del estado para exponer cuál es la situación de nuestra comunidad autónoma y la problemática que genera especialmente como consecuencia a la imposición de la prohibición de desarrollar ofertas públicas de empleo

veinte barra dos mil once de medidas urgentes en materia presupuestaria tributaria y financiera para la corrección del déficit público

horrela jasotzen du por lo tanto y a la vista de lo planteado por el resto de gruposy viendo que coincidimos en la necesidad por un lado de elaborar un plan de empleo para la administración general vasca administración vasca y en la necesidad de analizar dentro del marco normativo vigente la posibilidad de convocar

señora presidenta señoras y señores parlamentarios señores miembros del gobierno

nosotros votaremos a favor de la transacción de la proposición no de ley acordada entre el grupo proponente y el grupo que apoya al gobierno vamos nosotros es que lo consideremos lo normal en la acción

de cualquier administración en relación con el mantenimiento

del mismo del empleo orientado hacía el buen desarrollo de los servicios públicos pues estamos hablando de una cuestión normal de una podríamos decir de una obviedad pero

hay que estar ahí hay que incidir en lo que es ese empleo orientado a los servicios públicos la permanente adecuación a las necesidades de todo tipo

dinámica también lo identifican las propias administraciones lo hacen los sindicatos

que se analicen y que se tomen medidas orientadas al futuro en relación con las necesidades de todo tipo vuelvo a decir es una cuestión que es lo normal de cualquier departamento de gestión interna de un gobierno de una administración siempre es bueno hablar de gestión administrativa

hablar en ese sentido y a renglón seguido de las tecnologías de los recursos de los servicios más y mejor

importante también décimos y yo creo que es con razón porque lo décimos todos que tenemos la generación de jóvenes mejor preparada de la historia así que no debe de existir desde nuestro punto de vista ningún miedo en los relevos al revés tenemos que verlos como una mejora cualitativa sin ningún género de dudas en relación con lo que vaya a ser eso conformar estructuras

mejor preparadas seguramente que en el pasado y yo creo que lo relativo al conocimiento de la plantilla no debe basarse tanto en una experiencia

en la formación y en el reciclaje permanente por ello lo importante son planes de formación permanente adecuados al momento planes de formación permanente adecuados al puesto planes de formación permanente que sean útiles

en definitiva es lo que hay que hacer la enmienda habla de elaborar un plan de empleo que diseñe una organización a medio largo plazo respondiendo a las necesidades de demanda de servicios actuales garantizando por medio de una inmediata y consensuada planificación del relevo generacional es normal vuelvo a decir ese relevo generacional va a ser bueno porque tenemos las generaciones mejores preparadas de nuestra historia así que en ese sentido no hay que

lo correspondiente a analizar dentro del marco normativo la posibilidad de convocar en este mismo año dos mil catorce en la medida de lo posible o que se identifiquen esas posibilidades

estará bien nosotros hemos echado de menos un punto

con hablar de la formación en ese plan que se hable de una formación es decir hemos hablado

de la experiencia yo creo que es bueno que se hubiese hablado de la formación esperemos

permanente y desde luego y no nos cabe ninguna duda que si es un plan como dios manda tendrá que tener abordar otro tipo de cuestiones es decir

que las hay y que se identifican que son las orientadas a superar las insuficiencias y también como hablamos en el ámbito de lo político también aquí

ese plan deberá abordar otras cuestiones es decir eliminar también duplicidades eso desde luego todas esas cuestiones no solamente las que tienen que ver con los relevos con los planes a medio largo plazo sino también entender que ese plan sea proactivo en formación en superar ineficiencias e insuficiencias en eliminar duplicidades pues deberá formar parte de ese plan en el diseño del empleo público

muchas gracias señora presidenta eskerrik asko barrio jauna

usted señor barrio la preocupación por la formación permanente de los trabajadores públicos pero lo cierto es que no he querido centrar hoy el debate en esa cuestión porque se produjo la transferencia la legislatura pasada de todo el ámbito de la formación de los trabajadores públicos

se planifica anualmente me consta que está hecho supongo que lo habrán adaptado a las necesidades y además hay un plan de innovación pública que también lleva

en el seno de ese plan de innovación pública lleva la parte de adaptación

nuevas necesidades de la administración electrónica de la transparencia

y la sugerencia de que hay un número determinado de puestos de trabajo de la administración general que deben de ser adaptados a esa nueva administración y por lo tanto también la

para que se adapten a sus nuevas tareas y funciones lamento que a la portavoz de eh bildu le haya parecido poco concreta esta propuesta

a mí yo desde luego lo que ejerzo es la tarea de control hemos conocido que tienen ya un trabajador destinado a estas tareas de elaborar y coordinar este plan de empleo público

en esa relación bilateral que mantienen con el gobierno de españa y con el partido popular consigamos tener una tasa de reposición superior a la establecida por la legalidad

ope en este año dos mil catorce agradecer al resto de grupos el apoyo que van a dar a esta iniciativa del grupo socialista y nada más muchas gracias eskerrik asko mendia andrea

vemos que no sé si consciente o inconscientemente pero el título de la iniciativa no corresponde con al final la enmienda pactada

el solicitar al gobierno un plan de reorganización

planificación del empleo de la administración

analizar o valorar las opes que tienen que salir en qué ámbitos

cuándo y en qué términos

de otra forma nosotros seguimos pensando que nuestra enmienda es más concreta que propone medidas más concretas que ayudarán

vasca como a generar nuevo empleo y a rejuvenecer la plantilla de la administración y por eso

una serie de medidas en relación con la jubilación anticipada renuncia incentivada a la condición de empleado

pero qué paso pues que posteriormente en la ley veintisiete barra dos mil once

se modificó la regulación tanto de la edad de jubilación como la regulación de la de jubilación anticipada a la vista de la legislación citada esaten du akordioak literalki ari naiz irakurtzen se advierte que el requisito para acceder a la jubilación

eta beste aldetik esaten du para poder acceder a la jubilación anticipada por voluntad de la persona trabajadora se exige tener cumplida una edad que sea inferior en dos años como máximo a la edad de jubilación eta abar eta abar betekizun zorrotzak

el plan estratégico de recursos humanos de la diputación foral de gipuzkoa con base en la regulación anterior hacía referencia únicamente al requisito del cumplimiento de la edad por ello a la vista de las modificaciones legislativas referentes

proceda adecuar la regulación de estas medidas para acceder tanto a la jubilación anticipada como a la renuncia incentivada

a lo largo del mes de septiembre de dos mil trece se ha desarrollado un proceso de negociación

que ha finalizado sin acuerdo eta gero dekretazoak alboratzeko eskatzen dituzu hemen

bukatzen du esaten a la vista de todo lo expuesto previa negociación con la representación del personal y sin acuerdo

previa deliberación el consejo de gobierno foral acuerda modificar las medidas tanto de acceso de a la jubilación como

esaten du es inaceptable la actitud adoptada por la diputación foral de gipuzkoa respecto a sus personas trabajadoras

se están tomando decisiones unilaterales a veces y sin acuerdo otras veces en temas básicos aipatzen ditu besteak beste se ha modificado el plan estratégico de recursos humanos de la diputación foral de gipuzkoa en cuanto a

se están haciendo modificaciones de la rpt donde se amortizan puestos de trabajo de niveles inferiores hay una reducción del número total de puestos de la estructura

y lo que es peor sin llegar a acuerdos ez aipatzearren beste batzuk erakundea ixteko erabakia hartu zenean moduan

muchas gracias señora presidenta hemos presentado esta proposición

reafirmando la vigencia del concierto económico sobre todo después del último acuerdo que ha sido ratificado en las cortes generales del mes de diciembre entre las administraciones vascas y el gobierno central

que supone mayores competencias para las administraciones forales fiscales y mayores competencias y mayores recursos también para las mismas

y lo que queríamos hacerlo además en base a dos motivos primordiales uno es evidente que hoy el concierto económico está recogido y salvaguardado por la constitución española y por el estatuto de

que además tiene ya su pleno encaje en europa después de la sentencia del tribunal de luxemburgo y sin embargo cuando planteamos la proposición

el concierto económico sufre determinadas críticas de determinada gente

hay algunos que se apuntan al carro y es evidente también que tenemos que hacer autocrítica de por qué fuera del país vasco

unas veces por el mal uso que hemos hecho y el ejemplo más palpable fue el caso de las vacaciones fiscales

pero lo cierto es que lo que más se suele confundir fuera es el concierto económico con la ley del cupo que son dos leyes distintas como todo el mundo sabe

cuando se habla de concierto económico se habla de cupo y es evidente que hoy existen ciertas discrepancias en cuanto al cupo desde hace cinco años pero yo en esta materia lo que tengo que decirles a todos los representantes vascos en esta cámara es que en fin supongo que lo mismo que cuando el partido popular gobierna incluso con mayoría absoluta se renueva el concierto económico se amplían las competencias del gobierno económico lo cual demuestra

y una apuesta clara de mí partido por el concierto económico y su figura pues no tengo tampoco ninguna duda que las desavenencias que crearon otros

y conseguiremos llegar también a un acuerdo en la materia del cupo por lo menos esperemos que cuanto antes hay algunas críticas muy curiosas que se han hecho recientemente en el congreso de los diputados diciendo que es que es una figura vetusta vieja anciana y no sé qué adjetivos más de la misma materia y sin embargo

lo plantean parecen desconocer porque luego sí dicen que son muy europeístas que europa se está construyendo y se está financiando con un modelo que es

pero es evidente que cada estado que pertenece a la unión europea recauda sus impuestos que tiene sus competencias y que cada uno de ellos hace la aportación que le corresponde en función de los acuerdos que tienen a esa aportación se le puede llamar aportación se le puede llamar cupo

hoy en europa de financiación de la unión europea es el mismo que fija el concierto económico y por lo tanto no parece que sea esa una gran crítica el decir que es un instrumento muy viejo que en fin tampoco es tan viejo tener más de cien años por lo menos en cuanto a leyes o entramados institucionales

yo lo que quiero poner en valor hoy es el acuerdo que tenemos en la transacción que tenemos y lo que espero es que evidentemente me gustaría que la cámara por unanimidad

reconociera la vigencia del concierto económico reconociera su encaje constitucional y en europa reconociera que tiene instrumentos solidarios suficientes reconocidos en la propia ley del concierto y no se tergiversara fuera para plantear otros temas y que por lo tanto pudiéramos tener un acuerdo por unanimidad en este tema ya digo que me gustaría pero ya lo veremos

sí gracias presidenta evidentemente señor damborenea como usted sabe perfectamente no va a haber

parece que el partido popular está preocupado por el mantenimiento presente y futuro del sistema de concierto económico creo que el partido popular sabe perfectamente que cada vez hay más voces que se alzan en contra de este sistema que sostiene

que son indudables y que están ahí creo que el partido popular

señala que efectivamente aquí en euskadi ya existe un partido político que se llama upyd y que tiene representación parlamentaria

los privilegios económicos que supone este sistema y yo entiendo que en parte el partido popular presenta esta iniciativa para tratar de acorralar quizás a upyd por lo tanto existe una preocupación entre los diferentes partidos políticos en relación al mantenimiento

este sistema no tiene excesivo futuro no solamente porque lo diga upyd y por los argumentos que habitualmente hemos planteado aquí y en otras cámaras sino porque

entre distintos círculos intelectuales de estudiosos de personas que saben sobre la cuestión que vienen a decir y que están planteando en los últimos tiempos que efectivamente este sistema rompe la igualdad que debería existir en estado que quisiera llamarse como plenamente democrático yo querría hacer una serie de preguntas en relación a esta cuestión si este sistema

y viene tan bien a euskadi y nos favorece tanto a los vascos por qué ustedes especialmente los partidos políticos que tienen representación en otras cámaras autonómicas

pueda implantarse también en otras comunidades autónomas es decir también este sistema en otras comunidades autónomas otorgaría esa serie de beneficios esa serie de potencialidades que ustedes resaltan en la transaccional que han firmado

no lo han hecho por qué no presentan ustedes iniciativas parlamentarias como suelen hacer

a través de proposiciones no de ley o proposiciones de ley para que este mismo sistema pueda ser también posible en otras comunidades autónomas por qué

no lo ha propuesto bien el gobierno de españa gobernado por el partido socialista o el propio gobierno de españa gobernado o en manos del partido socialista por qué no proponen que este sistema puede extenderse también al resto de comunidades autónomas si tan beneficioso es para la economía

en beneficio también de la economía del conjunto del país si es tan extraordinario

y además no implica ningún tipo de beneficio adicional por qué se lo niegan a otras comunidades autónomas no es que no propongan su implantación en otras comunidades autónomas sino que incluso se lo niegan a otras comunidades autónomas que en los últimos tiempos han venido a plantear la necesidad de tener un sistema semejante al del concierto económico por ejemplo

en su momento y no me refiero hace treinta años por qué se lo negaron en los últimos años a cataluña por qué se lo negaron por qué el gobierno de españa dijo que era absolutamente

en fin querría que ustedes me respondieran a estas preguntas para que el debate de hoy sirva al menos para algo lo cierto es que en los últimos tiempos ha habido representantes políticos de muchos partidos políticos distintos ha habido declaraciones de representantes institucionales estudios planteados y realizados por especialistas

por dirigentes de todas las geografías españolas que han venido a señalar ya digo con estudios y con datos que efectivamente el concierto económico supone un

a los ciudadanos vascos lo mismo que el convenio navarro beneficia también a los ciudadanos navarros en relación con los restantes ciudadanos españoles como nosotros somos un partido progresista que defiende la igualdad que no la uniformidad nosotros lo que hacemos es criticar este tipo de sistema

ya digo hay técnicos que conocen la cuestión y que han venido en los últimos tiempos planteando estudios sobre la materia puedo citar

o a francisco de la torre han realizado todos ellos estudios serios sobre la cuestión

y han incidido en los últimos tiempos en esta cuestión ya un tal antonio maría aguirre en el año dos mil cinco miembro entonces del comité nacional del partido socialista de euskadi

aniversario del concierto económico vasco escribía un artículo en el que afirmaba los socialistas vascos tenemos la oportunidad de impulsar una modificación del concierto económico para hacerlo solidario con el resto de españa reconociendo por lo tanto que el sistema de concierto económico a través del cálculo del cupo era decía que nuestra aportación al estado no respeta los principios de igualdad progresividad y solidaridad establecidos por la constitución española y decía literalmente que los socialistas vascos tenemos que preguntarnos si queremos ejercer realmente el socialismo siguiendo los principios según los cuales se fundó el partido político más antiguo

quien entonces era un miembro del comité nacional del partido socialista de euskadi pero es que miembros también de su partido político señor damborenea han venido a plantear en los últimos tiempos

se preguntaba sí tiene sentido que las comunidades más ricas refiriéndose a navarra y país vasco aporten menos que el resto de las comunidades autónomas a la solidaridad del conjunto del país los socialistas andaluces a través del presidente del partido socialista entonces

debe estar excluida de la solidaridad porque es mandato de la constitución refiriéndose evidentemente a esta cuestión el líder de los socialistas catalanes

pidió la eliminación del concierto económico dijo que si queremos una financiación justa empecemos por eliminar de la constitución los privilegios que hoy existen

mostró su deseo de ser solidario con el resto del país pero respetando nuestra singularidad por lo tanto reconociendo que los sistemas actuales no eran solidarios

afirmaba en junio de dos mil trece que el concierto económico no está en cuestión cierto

hay que abordar una financiación solidaria señalando por lo tanto que la financiación que se lleva a cabo en estos momentos como consecuencia del cálculo del cupo no es solidaria en fin el actual portavoz socialista el señor pastor

los vascos no pagamos nada al resto de los españoles quizás pueda decir ahora que no dijo eso pero lo dijo delante mío sentado porque era una tertulia que realizamos en radio euskadi el señor maroto alcalde de vitoria afirmó en la campaña electoral vasca

literalmente porque estaba sentado junto a mí que soy un hombre pragmático no nos interesa la independencia ya tenemos el concierto económico que nos beneficia

autónoma de madrid criticando el sistema de concierto económico y el cálculo del cupo no es de upyd muchas de estas personas son miembros del partido popular

pere navarro primer secretario del partido socialista catalán dijo que el concierto vasco y el convenio navarro son un privilegio incompatible con una financiación justa

pere navarro pide quitar los privilegios de euskadi y navarra

le desautoriza el concierto vasco fractura al partido socialista obrero español

de carreras uno de los nombres propuestos por el partido socialista acertadamente además para que pueda comparecer en la ponencia de autogobierno escribía un artículo hace algunos meses donde decía que lo que debería cesar es la privilegiada financiación de las comunidades vasca y navarra

hoy tan inconstitucional por discriminatoria como lo sería que la generalitat fuera financiada por el sistema de concierto económico

una de las personas propuestas muy acertadamente por el partido socialista para que pueda comparecer en esta cámara en la ponencia o el propio señor javier tajadura otra de las personas que ha propuesto acertadamente además el partido socialista para que pueda poner para que pueda comparecer en esa ponencia de autogobierno cuando dice que la coexistencia de dos modelos diferentes el de las comunidades forales

común es el problema fundamental de nuestro estado autonómico

del nuevo estatuto de cataluña escribía también que la financiación por habitante del país vasco es superior en un sesenta por ciento a la media de las comunidades del régimen común artículos parecidos y opiniones semejantes las han dado personas tan relevantes como

una de las personas que ha propuesto muy acertadamente el partido popular para que pueda comparecer en esa

según el señor damborenea y seguramente según la mayoría de ustedes

no entiende nada no entiende el sistema de concierto económico no entiende el sistema de cálculo del cupo sin embargo ustedes los traen acertadamente a este parlamento para que puedan comparecer en la ponencia de autogobierno he realizado una serie de preguntas

a personas distintas personas que pertenecen en algún caso a distintos partidos políticos que han escrito estas cosas en los últimos años

y luego seguimos dialogando y discutiendo sobre este asunto tan importante eskerrik asko maneiro jauna eh bildu taldearen ordezkaria den pinedo andreak dauka hitza

bere hitzetan esaten zuen la puesta en cuestión del concierto económico se está produciendo estos días dieciocho de junio es importante que el parlamento vasco

ahora y no dentro de varios meses baina tira hemen gaude apirilean gai hau

presidenta señorías he estado atento a la presentación de la iniciativa por parte del señor damborenea

cómo nos la iba a presentar cómo nos la iba a justificar teniendo en cuenta que esta es una iniciativa que se hizo el dieciocho de junio del año dos mil trece

y que parece ser que la mesa en este caso no solo aceptó sino que fue visionaria

diez meses traerla pero es que cuando la trae a los diez meses invoca

el concierto económico para decir que esta es la razón el momento el motivo por el que se presenta ahora con lo cual doble visionario es usted también un visionario porque

el dieciocho de junio ya se anticipó a lo que entonces ni tan siquiera se hablaba que podría ser después un acuerdo además muy importante

de las haciendas vascas y que por lo tanto compartiendo esos recursos puedan tener setenta u ochenta millónes más aproximadamente

en recursos que es lo que se ha calculado que significan la transferencia de esos ocho impuestos pues me parece que es muy importante desde el punto de vista económico

su impronta la cosa porque es un pacto

y curiosamente no se han derrumbado las estructuras democráticas del estado no ha pasado absolutamente nada

nada ni a poner en tela de juicio a la democracia del país y parece que la posibilidad de acuerdos transversales

que son posibles por supuesto siempre que participe el partido popular aspiramos los demás partidos a poder hacer acuerdos transversales también sin excesiva crítica del partido popular allá cuando corresponda

curiosas anecdóticas etcétera se nos plantea una

para poner en valor el concierto económico y para decir que somos unos incomprendidos y además para

lo he visto en más de una intervención porque parece ser que el concierto económico es una figura legislativa institucional que no debe estar sometida a criticas que es intocable en este país donde

donde se critica todo y algunas veces de qué formas en fin yo creo que hacer las cosas con normalidad y por lo tanto la normalidad sería primero que no estuviéramos tratando una

la siguiente normalidad es que no tuviesemos que venir aquí a sacar las hemerotecas y a recordar las citas de unos y de otros como si ese fuera el ejercicio en fin para el que está predestinado este parlamento

usted ha dado un paso que tampoco no esta mal que es releer textos de socialistas

a su comprensión de la política ahora hace falta que de vez en cuando también actúe como los socialistas porque eso le elevará y le mejorará enormemente pero bueno hay que empezar como en la escuela paso a paso la m con la a ma y luego

de debatirlo en estos momentos aquí en el calor de la política española

si tiene alguna importancia si tiene alguna virtualidad yo creo que es el de rescatar repetir recordar que la constitución española permite hacer esto

permite hacer una herramienta política tan singular tan específica como la del concierto económico y esto me parece que es un valor extraordinario que demuestra la potencialidad primero de la constitución

un autogobierno tan elevado como el que tiene el país vasco y un concierto económico que le da ese instrumento de capacidad fiscal de capacidad financiera para poder ejecutar esas políticas las cuales tiene como competencia por lo tanto

ante una constitución que abre enormes posibilidades y en estos momentos en los que se pone muy en cuestión la propia constitución es bueno recordar que tiene una gran potencialidad en segundo lugar

un autogobierno tan importante que es envidia de muchos que es motivo de crítica motivo de valoración porque efectivamente da una capacidad

y de hacer la política desde una parte del territorio del conjunto del país que parece

importante porque la vivimos porque mediante ese autogobierno mediante ese concierto tenemos una determinada calidad de vida pero además es importante porque

que hay muchas formas de trabajar de hacer la política y por supuesto de decidir es decir

y esa gran capacidad del autogobierno lo que demuestra es que hay un gran ámbito de decisión política en la política del país en la política de los partidos

el autogobierno la constitución lo que pone de manifiesto es que cuando la política quiere puede cuando la política

busca el camino del acercamiento busca el camino del acuerdo hace acuerdos de una importancia de una singularidad y de un nivel como el que estamos hablando

es un instrumento o una herramienta útil sobre esto se ha pronunciado recientemente el tribunal constitucional que también es una pieza

de ese sistema constitucional cuando dice en relación con la iniciativa de cataluña o de los nacionalistas catalanes que la soberanía es una soberanía compartida por todo el pueblo español y que es en el ámbito de la política donde se tienen que dirimir y resolver

entre distintas propuestas políticas de los distintos grupos políticos

de nuestra arquitectura institucional de nuestra capacidad política de nuestro ámbito de decisión política de nuestra capacidad para decidir políticamente

el país cómo queremos hacer sus leyes para qué queremos que sirvan y para qué queremos que sean útiles

en todo caso el elemento central o el elemento importante de reflexión y de recuerdo que podemos hacer en esta

que nos ha presentado hoy el señor damborenea

tiene su tiempo en barrica y su tiempo el botella y por lo tanto será el momento de descorcharla disfrutemos de este descorche pero

de fondo de las cosas y no nos quedemos en las anécdotas en los comentarios en las opiniones particulares a las que todo el mundo tiene derecho

el señor maneiro por eso como además nos ha felicitado

a la hora de proponer a personas relevantes que puedan ayudar a hacer una reflexión sobre el autogobierno en la ponencia de autogobierno yo

maneiro que él no tiene porqué acertar tanto como nosotros

a la hora de hacer propuestas pues también será bueno para todos muchas gracias eskerrik asko prieto jauna

fruto de esa negociación bilateral se ha llegado a un acuerdo que pone de manifiesto la capacidad de adaptación de una institución

moderna que es flexible como es el actual concierto económico y además todas las instituciones implicadas han actuado con responsabilidad política es tan flexible y moderna que ha permitido que la actualización haya sido aprobada y suscrita

muy distintas adscripciones políticas esta circunstancia sitúa al concierto económico como elemento central

concitando un amplísimo consenso político y social algo que se debe destacar decíamos que es una especificidad vasca

del país vasco en las cargas generales del estado instrumento de autogobierno el mejor del que hemos podido dotarnos es la mejor

erreminta hau ondo kudeatzeari esker todo ello se debe en gran medida a la buena gestión de este instrumento y a las competencias que tenemos asumidas carácter solidario el concierto económico no es ningún privilegio ni conculca en ningún caso

no rompe nada señor maneiro el tribunal supremo de españa dictó ocho sentencias en dos mil doce que usted probablemente habrá leído

entiendo que también las sentencias del tribunal supremo usted las habrá leído

ninguna conculcación del principio de solidaridad tampoco de los artículos ciento treinta y ocho y ciento treinta y nueve de la constitución relativos a que no tiene que haber privilegios

el fondo de compensación interterritorial es el mecanismo del sistema español para dar respuesta a la solidaridad entre territorios y

a ese fondo con el índice de imputación que nos corresponde el seis coma veinticuatro por ciento en la parte que determine el estado como carga no asumida

que tuvimos en octubre querríamos destacar porque a diferencia digo porque la iniciativa original presentada

se aborda esta cuestión querríamos destacar el necesario fomento y divulgación del conocimiento del concierto económico que es el cuarto punto que hemos metido en la enmienda transaccional que hemos firmado entre el grupo proponente el partido socialista y nuestro grupo parlamentario

muchas gracias señora presidenta

uno y no me vale que me diga usted que es que aquí se puede disponer en un momento determinado de más dinero

porque eso responderá a la presión fiscal si es más o es menos en un sitio o en otro lo mismo que un ayuntamiento frente a otro ayuntamiento responderá a si las ordenanzas fiscales de un ayuntamiento son iguales a o no al del ayuntamiento de al lado

que rompe la igualdad pero porque usted lo diga se lo han dicho a usted ninguna sentencia de ningún tribunal ha dicho eso sino todo lo contrario sino todo lo contrario

nos dice usted que por qué no se implanta en otras comunidades autónomas usted sabe que en el año mil novecientos noventa y siete si yo no recuerdo mal gobernando el señor aznar

ley orgánica de financiación de comunidades autónomas por la cual todas las comunidades autónomas empezaron a tener capacidad fiscal y por lo tanto capacidad de modificar impuestos de hecho incluso nosotros no teníamos capacidad en el irpf y todas las demás comunidades autónomas

es decir esto no es novedoso la única diferencia que existe es las competencias diferentes entre unos y otros y que el que recauda

sigue siendo la agencia tributaria pero esa es la única diferencia

que recauda por eso no pagan cupo porque como recauda el estado les ingresa el dinero

en los impuestos y en la competencia que tienen con sus impuestos entonces no me plantee usted que esto es una cosa novedosa porque no se traslada no se preocupe usted porque preveo que se irá trasladando cada vez más

porque a lo mejor resulta que es que en esas otras comunidades también quieren tener mayores capacidades fiscales y

no es que usted desconozca el concierto económico y lo que es la ley del cupo lo que me preocupa es que conociéndolo haga este discurso

pero como ya le dije una vez ya sé que no lo está haciendo para aquí sino que lo hace para allí sí sí lo hace para allí porque usted piensa que eso vende

y me dice que cataluña por qué no se le da a cataluña cataluña nunca a solicitado el concierto económico ni cuando se negoció la constitución ni cuando se aprobó el estatut y si no léaselo usted y verá que no tiene nada que ver con el concierto económico lo que estaba aprobado allí y por cierto los comparecientes que traemos nosotros no tienen por qué ser del partido popular yo no sé si usted sus comparecientes tienen que ser todos de su ideología nosotros hemos planteado que venga gente que no es del partido y por lo tanto no tiene por qué coincidir con el que plantee el partido popular

dice que no es independentista oiga es que es normal es del pp no sé que es lo que le molesta a usted y que además está contento y de acuerdo con el concierto económico es que es del pp oiga

me lo repite y no sé por qué motivo ni por qué razón

en el mes de junio del año pasado oiga sí y no se debatió

y por lo tanto se iba después del verano y por qué nos ha parecido conveniente traerlo ahora

por una cosa muy sencilla porque cuatro administraciones no partidos no partidos señor prieto

cuatro administraciones con cuatro gobiernos distintos han sido capaces de llegar a un acuerdo sin unilateralidades

y de cada uno plantea lo que quiere y cómo quiere y eso es lo que se tiene que hacer nos ha parecido que en fin que el acuerdo del concierto económico

aprobado y ratificado en las cortes generales por casi todo el arco parlamentario lo que es es una muestra de cómo se pueden hacer las cosas llegando a acuerdo y no

sí gracias presidenta yo en primer lugar quiero dar las gracias de manera muy sincera al señor damborenea

a la cámara porque nos ha dado otra vez la oportunidad de explicar cuál es la postura de upyd sobre la cuestión y de paso dejarles a ustedes en evidencia

porque efectivamente no es solo upyd quien plantea estas cuestiones sino que son personas estudiosas técnicas en la materia que han venido a plantear estas mismas cuestiones dentro de euskadi y fuera de euskadi y yo he querido citar

algunas son miembros destacados o han sido miembros destacados de sus propios partidos políticos y luego he citado a personas independientes a intelectuales a personas que han estudiado el asunto y cuyas declaraciones he querido citar porque me parecen relevantes porque al fin y al cabo son personas en las que ustedes depositan su confianza

en la ponencia de autogobierno y que también merecen nuestra confianza porque efectivamente son personas muchas de ellas que han demostrado durante largos años no solamente su independencia sino un trabajo riguroso sobre la cuestión y por eso he citado yo a todas estas personas para no citar únicamente los planteamientos que viene defendiendo upyd

miembros también de sus propios partidos políticos han venido a plantear estas mismas ideas y por otro lado estudiosos y personas que saben muchísimo de la materia y que

en los últimos años hay una serie de privilegios que son evidentes por un lado se exime a las comunidades forales de contribuir al sistema de nivelación interregional a través del que el estado aporta recursos a las comunidades de menor renta para que estas puedan prestar servicios similares a los territorios más ricos

no transferidas al país vasco está sesgada a la baja y tres el ajuste técnico que se realiza para conseguir que cada administración se quede

a favor de las comunidades forales y el problema surge porque los cálculos necesarios para realizar el ajuste se hacen utilizando valores de los coeficientes que recogen el peso de estas comunidades

con los reales esto es lo que vienen a decir todos los estudios que se han realizado sobre la cuestión en los últimos años personas que saben de lo que están hablando

en fin una cosa es tener capacidad fiscal señor damborenea y otra que este sistema

estén dispuestos a defender que el sistema de concierto económico y el cálculo del cupo pueda instaurarse en otras comunidades autónomas al revés ustedes han dicho que es inviable y con razón es inviable porque la suma

más que cien por lo tanto no se trata de extender este sistema privilegiado a otras comunidades autónomas sino de que no haya sistemas privilegiados

en ninguna parte del país que haya máxima igualdad ciudadana máxima igualdad fiscal y esto es lo que nosotros proponemos con nuestra enmienda de totalidad

que se calcule bien el cupo y por otro lado

puesto que no se calcula bien el cupo se modifique la constitución española para ir hacia un estado federal igualitario eso sí es progresismo

defender la igualdad sí es progresismo defender lo que está defendiendo upyd en este parlamento sí es progresismo sí es defender la igualdad sí es defender la solidaridad lo demás son

de la verdad a la hora de los hechos el único partido político que en esta cuestión defiende la igualdad y defiende el progresismo es upyd por lo tanto queremos pagar lo que nos correspondería pagar dentro de un estado que fuera igualitario

la igualdad también la fiscal queremos aportar como los demás a la solidaridad interterritorial no queremos ni pagar más ni pagar menos queremos un cálculo justo y un sistema claro transparente que garantice igualdad del conjunto de los ciudadanos por eso criticamos este sistema aquí y fuera de euskadi por eso criticamos el sistema de convenio navarro en navarra

y por eso criticamos que se plantee en el caso de que se quisiera plantear que este sistema pudiera instaurarse en otras comunidades autónomas no solamente porque es inviable sino porque sería profundamente injusto por lo tanto defendemos

por lo que se ve están ustedes otra vez todos de acuerdo eh bildu de la mano del pp de la mano del partido nacionalista vasco y de la mano del partido socialista de euskadi de lo que en nuestra opinión y en opinión de técnicos y de otras personas que pertenecen a otros partidos políticos es un sistema que lo que hace es consolidar

yo creo que en mi exposición previa ha quedado claro usted ha intentado luego buscarlo

todas las administraciones pero bueno ahí se queda

al concierto que sobre todo vienen desde fuera y desde el desconocimiento y que por lo tanto habría que fomentar el conocimiento del concierto económico entre todos y todas no estaría mal que empezará por su propia casa señor damborenea porque mientras usted aquí hace una defensa acérrima del concierto económico desde su foralismo mientras empiezan ustedes la precampaña de las

en la gran vía de bilbao defendiendo el concierto económico resulta que en su partido político es donde tienen ustedes un montón de personas diciendo que el concierto económico es un privilegio y apoyando

las capacidades del concierto económico sobre su singularidad

estaremos más tranquilos todos sin ver a diferentes presidentes de autonomías del partido popular atacando deliberadamente al concierto económico señor maneiro privilegios desigualdades

hace seis meses que me parece bien porque evidentemente usted sabrá por qué las utiliza y yo no voy a poner en duda

pero señor maneiro cuando usted me dice que hay muchas personas que saben de lo que se está hablando muchos académicos y académicas técnicos y técnicas profesores y profesoras universitarias que dicen que el concierto económico es un privilegio y ampara las desigualdades le digo que yo le presento los mismos y más

no si es que no voy a empezar en eso pero usted lo sabe señor maneiro entonces si queremos entrar aquí en una carrera de cuántos hay en contra y cuántos a favor

es su discurso constante todo el día hablándonos de lo mismo se lo dije hace seis meses cuando usted trajo la iniciativa y no el señor damborenea hace seis meses la trajo usted en esta ocasión el señor damborenea

tienen que aclarar su posición ante el concierto económico más allá del ebro

meter también se ha comentado que es la mejor herramienta de autogobierno que podemos tener

discrepo podrá ser la herramienta de autogobierno que hemos tenido que hemos utilizado que nos ha dotado de lo que nos ha dotado hasta fecha de hoy

previa pero discrepo de que sea la mejor herramienta de autogobierno que podemos tener

y lo hemos estado explicando en todos los diferentes foros donde se ha tratado el tema la propuesta que finalmente

eaj pnv han acordado sinceramente con su propuesta nos quedamos donde estamos que yo entiendo que al señor damborenea le parece

es donde quieren estar está ahí pero nos quedamos ahí y ahí no nos vamos a encontrar

ez du aurrera egiteko biderik jartzen eta beraz hor ez daukagu zer eginik y yo sí una cosa en el primer punto de su propuesta dicen que el concierto es un instrumento fundamental del sistema tributario propio de la comunidad autónoma

señorías esta afirmación es parcial parcial e incompleta porque como ustedes bien saben o deberían de saber el concierto económico que ya que lo van a dar a conocer

financiera y señorías esta parte financiera del concierto es tan importante o más que la parte fiscal

la parte financiera quizá sea porque la parte financiera del concierto a algunos les chirría eskerrik asko pinedo andrea

presidenta tres o cuatro puntualizaciones yo creo que una de las cosas que

autogobierno podemos en cierto modo exhibir o plantear como

recientemente hemos iniciado una reforma fiscal una reforma fiscal importante

importantes tanto en la fiscalidad en sí como en la lucha contra el fraude fiscal como en la coordinación entre instituciones

y que yo creo que demuestra y manifiesta que cuando de forma descentralizada como es este caso

hay instrumentos que se pueden utilizar correctamente adecuadamente en beneficio de la inmensa mayoría de la ciudadanía buscando cómo ayudar

sociedad que necesita de más recursos para atender necesidades sociales y necesidades económicas y este es un elemento es una parte del propio concierto y el propio autogobierno del que yo creo que debiéramos de sentirnos muy orgullosos entre otras cosas

concierto para poder trabajar con el autogobierno con el estatuto de autonomía todos nosotros nos hemos presentado a las elecciones hemos querido representar a la ciudadanía vasca hemos querido poner en valor los instrumentos políticos

y a esto hemos venido a este parlamento a poner en valor a esa ciudadanía a esa singularidad en algunos casos

en otros yo creo señor maneiro que usted sigue confundiendo lo que es igualdad con lo que es la uniformidad usted cree que no sigue confundiéndolo pero yo creo que sí y como esto es un debate pues yo intento hacerle ver

confunde yo creo que si el concierto fuera un privilegio si el concierto fuera

una forma de romper la desigualdad haga una retrospectiva y sitúese

se aprueba la ley del concierto usted se imagina a las fuerzas políticas que entonces llegaron a este acuerdo

se imagina a la constitución española que le dio

pensando en establecer un sistema de privilegio un sistema de desigualdad usted cree que todos los que estaban allí se conjuraron y conspiraron para poner en los tiempos un mecanismo de desigualdad de privilegio de agresión de unos frente a otros en fin yo creo que

intelectual mínimamente rigurosa con la historia mínimamente rigurosa con la pluralidad de este país con las diferentes formas

una sociedad usted sabe que no puede permanentemente insistir en ese discurso en ese discurso del privilegio y en ese discurso de la desigualdad usted sabe que el concierto económico no nos exime de ninguna responsabilidad el concierto económico traslada

parte de la capacidad fiscal de la capacidad recaudatoria la traslada al país vasco pero ese traslado no es para no ejercerlo es para abordarlo y además tal como establece el concierto económico en un sistema que en los propios principios que inspiran el concierto económico ya establece que tiene que ser similar que tiene que haber una correspondencia entre la fiscalidad

entre la harmonización del sistema fiscal entre españa y el país vasco por lo tanto efectivamente es una herramienta

de autonomía económica pero no es una herramienta de diferenciación necesariamente no es una herramienta de privilegio necesariamente porque ambos

a través de las suyas estamos concernidos y obligados a hacer una política pública una política de recursos una política

permanente error que sería bueno que lo fuera y por otro lado el propio concierto y el propio sistema fiscal español establece un sistema de compensación interterritorial por cierto debe de saber que ese sistema de compensación interterritorial lo decide unilateralmente el gobierno de españa y nadie plantea nada se está de acuerdo pero su cuantía su cuantía y por lo tanto cómo se compone cómo se participa en él

acude a él en la proporción que le corresponde de acuerdo a como así se hace en territorio común por lo tanto

sino también un sistema de solidaridad interterritorial que garantiza que si hay diferencias que pueden ser superables por ese mecanismo

yo creo que lo que queda pendiente del concierto y esto para el señor damborenea es que

en la política del partido popular a nivel de españa en relación con el concierto y en relación con una parte de nuestra capacidad financiera y es que el cupo

unilateralmente por el gobierno de españa doblando la cuantía de lo que significaba en el año dos mil trece al año dos mil catorce y que hoy todavía ese sea

el problema pendiente desde el dos mil siete oiga mire igual empiecen por arreglar el problema creado en el dos mil catorce que es un cupo unilateral

tres razones que se mencionan una y otra vez en los estudios que usted ha leído según los cuales se rompe la solidaridad y la igualdad

nosotros le hemos dicho que hay varias ocho sentencias dictadas por el tribunal supremo en el dos mil doce que dicen lo contrario

para nada es sospechoso de ser nacionalista con qué se queda usted con qué se queda usted con lo que dicen los estudios o con lo que dice las múltiples sentencias del tribunal supremo pinedo

nada no no nos chirríanada ni la parte tributaria ni la parte financiera

ha contado con el incondicional apoyo del partido nacionalista vasco la parte tributaria y la parte financiera ha hecho uso en beneficio de euskadi en beneficio de las vascas y los vascos

ha dado no nos chirría nada lo que tal vez pase es que a ustedes en esto como en otras muchas cosas les chirría mucho la brecha el gap enorme que hay entre su discurso

y entre lo que ustedes hacen hay una enorme brecha que va de que ustedes digan que es un conciertillo que es un instrumento que es un concierto que está agotado y luego utilizar ese concierto para hacer su supuesta política de izquierdas por cierto en un único territorio

y ahora se utiliza para hacer política de izquierdas en un solo territorio utilizando ese instrumento

que es un conciertillo y hacer uso de él para hacer su supuesta política de izquierdas eskerrik asko eskerrik asko gorospe